por un modelo propio en euskal herria aldarrikatzeko maiatzak

gertatu da asmatu egin zuten arrazoia zuten ya en el dos mil nueve se propuso un decálogo basado en la justicia social en la igualdad y en el reparto de la riqueza y del trabajo medidas relativas al mantenimiento del empleo frente a los despidos a garantizar unas condiciones dignas

aumentar las prestaciones sociales para responder al incremento del desempleo y la pobreza una política fiscal justa

más equitativo de la riqueza aumentar el gasto público en sanidad y educación para equipararlo a la media de los países europeos

a la situaciones de dependencia el acceso efectivo a una vivienda de alquiler

algunas de las propuestas que se realizaron en el dos mil nueve eta gobernuetatik justu kontrako politikak egiten jarraitu dute

beraien mesederako hartzen dituzue erabakiak se dan millónes a la banca para tapar

mientras la economía real sigue sin crédito dirutza hori guztia jaso ondoren

para repartir la miseria aceptando sumisamente el límite del déficit impuesto sin iniciativas propias

con escandalosos recortes en sanidad educación y servicios sociales jaurlaritzak ez du maila politikorik eman ez da gai izan

alternatiba bat gure ikuspuntutik justuagoa eta sozialagoa dena el gobierno no ha estado a la altura utilizando el victimismo como excusa de su impotencia e incapacidad de gestión

continúa responsabilizando a la oposición en un intento de ocultar sus propias carencias lotsagarria iruditzen zaigu azken egunotan

euskal herria bildu se autoexcluye de un pacto al apoyar la huelga del treinta de mayo

no tienen ninguna intención de modificar las políticas que nos han llevado a esta situación ni impulsar un camino que nos lleve a decidir aquí nuestras políticas y por eso le resultamos molestos

el modelo actual este modelo que nos ha traído a la situación que estamos

a la lógica de la austeridad y al recorte

un plan que responda a las necesidades de la sociedad de las personas de las que tanto hablamos y para eso que garantice

y para todas y el desarrollo de políticas de protección social un plan que contemple una reforma de la política fiscal en términos de justicia social que aborde la lucha contra el fraude fiscal con medidas eficaces y que contenga claras medidas contra

un plan de país en términos de soberanía que siente las bases de un nuevo modelo político económico y social

gracias presidenta señorías ha traído el grupo parlamentario eh bildu una iniciativa

era para debatir sobre la huelga y sobre ese

nuestro grupo se quiere centrar la huelga como instrumento de lucha

es un medio de presión que viene de tiempo atrás y que ya desde los días de la primera internacional se discutía sobre su procedencia

ha sido una discusión y un debate permanente en el seno de la izquierda en el día de hoy las condiciones reinantes que usted ha descrito perfectamente pueden justificar una huelga

no hay otra cosa que convocatorias de huelgas precisamente para responder a los muchos abusos que estamos asistiendo pero habría que plantearse

y a lo mejor a la vista de los hechos y de la entidad de la situación podríamos llegar a encontrar una justificación para una huelga general indefinida revolucionaria y de masas con lo cual la propuesta que ustedes traen solo sería

por lo tanto que está justificada la huelga puede estarlo naturalmente pero

que nuestra tradición y nuestra cultura política entiende que las instituciones no están para

elementos de conflicto a favor de una parte porque las instituciones entendemos que son de todos son de los trabajadores son de los empresarios y son de toda la ciudadanía

concernida por el conflicto pero además de que creemos que el parlamento y las instituciones en general no son el lugar para plantear apoyos expresos

entendemos que esta convocatoria tiene además otros elementos de reflexión que se contienen de algún modo en la enmienda que nosotros planteamos de totalidad y es que tenemos claro que esta convocatoria forma parte de una estrategia de hegemonía sindical y suele ocurrir

normalmente los intereses generales y el país queda subordinado justamente

es comprensible por tanto como digo una huelga que se convoque en estas circunstancias y por lo tanto nada diré

pero creo que el grupo proponente cuyo sindicato de referencia es lab del mismo modo que para el grupo socialista sus sindicatos de referencia son ugt y comisiones obreras

algunas reflexiones sobre su desempeño en esta convocatoria porque en primer lugar una convocatoria de huelga solo tiene éxito si logra los objetivos previstos

y ha admitido que las políticas no han cambiado por lo tanto no parece que hayan sido muy eficaces esas convocatorias como tales

con lo cual un elemento de lucha fundamental como es la huelga termina por devaluarse por vanalizarse y por perder y carecer

en segundo lugar sacrificar la unidad sindical en un momento de la historia excepcional como el que vivimos

aunque quizás no lo sea desde una óptica nacional sindicalista y en tercer lugar qué es ahora lo urgente usted lo ha dicho la negociación colectiva pero es que resulta que esa estrategia sindical que nosotros aquí denunciamos tiene alguna responsabilidad en el hecho de que no se hayan renovado

ahora estamos necesitados de llevar a cabo esa renovación de convenios y de blindarlos con un acuerdo interprofesional si es preciso porque

la que le pide al gobierno vasco que presione a confebask para que impulse un acuerdo interprofesional y blindar así los convenios colectivos pero hombre

que no acude al consejo de relaciones laborales que no se sienta en la mesa de diálogo social

por qué lo hace está allí no tiene que instarle al gobierno a que lo haga que vaya a esos foros donde tiene que plantear sus propias

que se dijo que se hacía para cambiar las políticas del gobierno cómo casa con la idea sindical convocante de que los pactos de empresas podrán sustituir de forma ideal

que estamos aquí denunciando mire hay muchos argumentos para justificar una huelga y también muchos argumentos para justificar el ahondar en la división sindical pero nos parece que no es coherente que no es congruente con la ofensiva neoliberal a la que nos enfrentamos creemos que la unidad sindical es importante

es lógico que haya diferencias ideológicas pero pese a ellas

el bien jurídico a proteger el elemento importante de la lucha de los trabajadores

en la unidad sindical y para qué la unidad sindical como décimos en nuestra enmienda

no planteamos que haya que perder de vista lo que son elementos de lucha tradicionales la confrontación y la movilización pero hay que saber

queda deslegitimado para reivindicar desde la movilización pura y simple cualquier cuestión porque al final a dónde nos lleva

de voluntad para ello el sindicalismo es fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores y como digo las diferencias ideológicos entre las organizaciones son lógicas también pero no es

terminar por convertir la huelga y la negociación colectiva que son dos elementos de lucha importante de los trabajadores los más importantes quizás

en un ritual inofensivo o convertir la negociación colectiva en una reliquia del pasado

como formula ideal por eso nosotros hemos planteado nuestra enmienda en la que instamos de nuevo a que el parlamento se reitere sobre el rechazo a todas las medidas de la reforma laboral y medidas concordantes e instamos también al parlamento a que

convoque la mesa de diálogo social este parlamentario es reiterativo y muy insistente sobre esta materia pero creemos

otra acción que las organizaciones sindicales puedan llevar a cabo en las calles y en los centros de trabajo es preciso también demostrar

al gobierno desde el parlamento solicitamos que se inste al gobierno a que se impulse esa mesa de diálogo social sin prejuzgar los resultados pero para que se expongan todas esas cuestiones

gatoz otras cosas que se dicen en la justificación no las compartimos en absoluto en concreto cuando se señala que otro modelo es posible especialmente si el modelo que se plantea es el de eh bildu o el de lab nosotros no compartimos el modelo económico de eh bildu

pero algo que es más importante no creemos tampoco que sea posible una salida a la vasca entendida esta salida como una especie de salida en solitario

además de otros muchos cambios que internamente deberían realizar deberían tener una visión y realizar un trabajo

o si se me permite la expresión más internacionalista tampoco compartimos el lema de la huelga por un modelo propio para euskal herria este lema

más bien somos partidarios de involucrarnos en todos los ámbitos decisorios para tratar de condicionar las políticas que irremediablemente nos afectan y nos afectarán

ni queremos ser una isla en el mundo no compartimos que esta huelga vaya a resolver ni uno solo de los problemas que padecemos desde luego no esta apoyada y planteada exclusivamente por los sindicatos nacionalistas azkeneko urte hauetan espainiako gobernuak aplikatu dituen politika ekonomikoak guk

para salir de la crisis tomar una serie medidas políticas y económicas determinadas exactamente esas que llevamos

y cuatro años en el parlamento vasco precisamente porque la política y especialmente la política económica que se ha venido aplicando en los últimos años nos está llevando

y hemos propuesto cambios concretos tanto en el congreso de los diputados como en este parlamento vasco y así lo seguiremos haciendo pensamos que nuestra obligación

es el trabajo institucional exactamente aquello a lo que nos dedicamos de modo que cuanto antes podamos salir de la crisis impulsar la actividad económica crear empleo digno y de calidad y abandonar las políticas de recortes sociales es lo que hemos venido haciendo y lo que seguiremos haciendo este es nuestro modo de arrimar el hombro y de cambiar las cosas este es nuestro modo

determinadas huelgas generales sino impulsar en las instituciones todas aquellas políticas y todos aquellos cambios que nos lleven a una situación mejor

a defender el estado del bienestar y a defender especialmente a los ciudadanos que peor lo están pasando en esta situación nosotros rechazamos la convocatoria de huelga promovida desde lab y ela y rechazamos llamar a los ciudadanos a que la secunden en conclusión rechazamos
la propuesta planteada por eh bildu gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos señora

no sé sabe si más que defender su propuesta pretendía llevar a cabo una continuidad del debate del punto anterior

el frustrado debate presupuestario porque ha hecho usted un repaso

a toda la política en general llevada a cabo por el gobierno vasco o que supuestamente y según ustedes tendría que llevar a cabo el gobierno vasco

nosotros nos vamos a referir concretamente a la propuesta que trae aquí que es una propuesta la relativa a la huelga

ya se ha debatido en otras ocasiones en esta cámara

fotografía fija de los argumentos que con anterioridad hemos utilizado los distintos grupos políticos

sino que sobre todo nos reporta absolutamente nada positivo

miméticamente argumentos por todos conocidos por todos expresados pero que no van a contribuir sino más bien creemos que lo contrario a solucionar

en la propuesta el apoyo de este parlamento y el llamamiento a la huelga general del próximo treinta de mayo en la justificación se pone de manifiesto que el parlamento vasco tiene que instar al gobierno vasco a que se asegure un empleo digno

y unas prestaciones sociales adecuadas a fin de garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas con este objetivo creo que todos los grupos estamos de acuerdo

se solicita para lograrlo desde luego el grupo popular no

económico y social que quieren cambiar lo que ustedes pretenden para conseguir este objetivo es que desde aquí se haga un llamamiento a la huelga general del día treinta

ni con esa huelga general usted ha dicho que estamos ante la sexta huelga general la cuarta en el último año como decía anteriormente estas no han aportado nada en post de la mejora de la economía nuestro razonamiento está fundamentado en datos

los datos a los que voy a hacer referencia a continuación son de ámbito nacional pero evidentemente y haciendo una sencilla extrapolación podemos darnos cuenta de que aunque sea de forma orientativa del alto coste que conlleva

vasca con un veinticinco por ciento de seguimiento

por ello entendemos que antes de convocar

y el apoyo a una huelga general se debieran de valorar las graves consecuencias que conlleva más aún en una coyuntura económica tan delicada como la que estamos atravesando

tienen su trasladación directa en la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas

de pequeños comercios que ven como ante su imposibilidad de trabajar sufren pérdidas acarrearle consecuencias irreversibles porque los pequeños empresarios los comerciantes los hosteleros los asalariados no disponen de cajas de resistencia que compensen las pérdidas que les ocasiona una jornada de huelga en muchas ocasiones impuesta es más que evidente que la ciudadanía a juicio de este grupo no está para huelgas

sino que los datos sobre el seguimiento de las huelgas celebradas en el ejercicio precedente así lo corroboran

de la inestimable colaboración de los eufemísticamente llamados piquetes informativos

esta tuvo tan solo un seguimiento de un veinticinco por ciento en el ámbito de la administración y un veinte por ciento en el sector privado

a pesar de la acción de los piquetes pseudoinformativos que vuelcan todo sus esfuerzos en tratar de impedir que la ciudadanía pueda ejercer

su legítimo derecho al trabajo porque como he dicho aquí en alguna otra ocasión evidentemente la huelga es un derecho pero no una obligación

y por contra quiera ejercer su derecho al trabajo también tiene que ver este derecho respetado y no nos llamemos a engaño

del papel que desempeñan estos piquetes en el ejercicio de su labor informativa coaccionando intimidando o a veces incluso llegando a la agresión a quienes legítimamente no secundan su convocatoria

solo por citar un ejemplo en la citada huelga general del pasado mes de septiembre se practicaron dieciocho detenciones y hubo cuatro policías heridos por lanzamientos de objetos contundentes

el país no está para huelgas porque lo que necesitamos es sumar sinergias acumular esfuerzos y sobre todo realizar un ejercicio colectivo de responsabilidad para tratar

para crear empleo pero no es menos evidente que algunos prefieren la pancarta la agitación social y las posiciones destructivas a mantener una postura constructiva que nos ayude a salir de la crisis

como tapadera y como subterfugio para plantear otro tipo de reivindicaciones así lo expresan ustedes en la iniciativa

su propio modelo modelo que responde más a reclamaciones de corte soberanista que de carácter laboral

está lleno de ataduras ideológicas está vinculado a determinados partidos políticos funcionan como correa de transmisión y como prolongación de los mismos

los sindicatos en este país son ajenos a cualquier tipo de asepsia ideológica como por el contrario sí sucede en la europa más avanzada

les obligaría a centrar su actividad sindical en cuestiones estrictamente laborales y no políticas que es lo que hacen actualmente el modelo sindical se ha desprestigiado a sí mismo además aquí se ha dicho por algún grupo que los sindicatos tienen de referencia un partido político

los trabajadores no los partidos políticos la proposición es un buen ejemplo de esa simbiosis y de esa confluencia de estrategia política y sindical

de un modelo propio que bajo la apariencia laboral lo que esconde es reivindicaciones claramente políticas y la estrategia se fundamenta principalmente

a lo que ustedes denominan como estado español como el único responsable de la situación que padecemos los vascos ustedes siguen la estrategia de cuanto peor mejor para que de esta manera presentar a la marca españa como culpable de la situación que vivimos este tipo de iniciativas no persigue mejorar las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora no pretenden desgastar al gobierno de turno el planteamiento

más allá de la crisis y del gobierno del partido popular son meros instrumentos para desprestigiar a la marca españa

y así utilizan la crisis como excusa para justificar un cambio de modelo político de modelo social de modelo económico como usted ha expresado en su intervención

no nos engañemos ustedes lo que quieren es un cambio de modelo de país y esa es la clave de la fundamental señora arrondo lo demás son fuegos de artificio y meros extras de acompañamiento también quiero expresarles que vivimos en un contexto político y económico globalizado como se lo ha dicho el señor maneiro que únicamente aglutinando esfuerzos vamos a conseguir salir de la crisis actual

por supuesto pero sin duda produce graves perjuicios para la economía y sin duda esta

les digo que más allá de pedir uniones a la huelga lo que se debe de pedir es el respeto de todos los derechos el de la huelga y el del trabajo de todos aquellos que el día treinta quieran ejercitarlo

lo que les digo es que solo saldremos de la actual crisis económica si somos capaces de aunar sinergias si somos capaces de sumar esfuerzos colectivos y sobre todo

en un localismo trasnochado caduco y malentendido que es lo que contiene la propuesta y que nosotros por supuesto no vamos a secundar nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

el empleo no se crea vía decreto pero sí creemos que desde el parlamento y el gobierno hemos de aprobar e impulsar iniciativas que favorezcan la creación

por lo tanto compartimos en que hemos de trabajar desde el parlamento

que permitan reactivar la economía para generar empleo y unas condiciones de trabajo dignas también como partido nacionalista que somos

en infinidad de ocasiones por un modelo propio por un marco propio de relaciones laborales para euskadi hau esanda garrantzitsua iruditzen zaigu bakoitzak

qué beneficios aportará se respetará el derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadoras que decidan acudir a sus puestos

se criticaba al gobierno por su inacción y hoy también se ha repetido cinco meses sin hacer nada se decía

dejó claro que el primer eje de su programa de gobierno pivotará sobre el empleo y la reactivación económica

su intención de seguir trabajando en este ámbito el gobierno ha tomado medidas concretas en este sentido en estos cinco primeros meses entre

así como ayudas financieras a pymes y autónomos para que puedan continuar con su actividad y mantener el empleo entre otras actuaciones parlamentuaren eskumenen artean

parecen más preocupados en hacer política ya se lo han dicho algún representante también eso sí

que en defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras por qué no se preocupan de establecer canales de diálogo para la resolución de los convenios colectivos en euskadi otra pregunta que también ha sido lanzada con anterioridad qué están haciendo para evitar

desde madrid así se vela por un modelo propio en euskal herria por utilizar el lema de la convocatoria zertarako greba deialdia

ez da bide egokia para terminar no entendemos por qué bildu pide al parlamento que haga un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la convocatoria de huelga no cree en el poder de convocatoria de los sindicatos y agentes convocantes es labor del parlamento convocar una huelga

no señora arrondo nuestra labor es trabajar buscar consensuar y acordar medidas

a fin de facilitar la generación de empleo euzko abertzaleak cree que la sociedad no entendería que con la que está cayendo

y respecto a la enmienda presentada por el partido socialista decir que tiene bastante poco que ver a nuestro juicio con la propuesta original y

que debatiremos el próximo viernes en comisión sobre la mesa de diálogo social que precisamente ha presentado
partido socialista por lo tanto ya tendremos tiempo de debatir en ese momento y no vamos a entrar ahora en dicho debate eskerrik asko eskerrik asko

interbentzio guztietan decía el representante del partido socialista

existen y me alegro de oír eso incluso para una huelga indefinida pero que las instituciones están para hacer política

la anterior intervención están para hacer política pero sobre todo para hacer política para que nadie ninguna persona de esta sociedad se sienta protegida y para hacer políticas basadas en la justicia social y hoy la realidad que estamos viviendo nos demuestra que eso no es así que las políticas que se vienen haciendo han llevado a que cada vez vivamos en un mundo más injusto que hace

que viva mal y que las organizaciones sindicales y muchos movimientos sociales tengan que

una huelga es para muchas cosas una huelga creo que

que las hemos secundado por lo menos sabemos que al día siguiente

pero también sabemos porque somos de izquierdas y porque hemos vivido muchas de estas circunstancias que la correlación de fuerzas que el camino se hace al andar y que una detrás de otra consigue al final a aquellos y a aquellas que no tienen escrúpulos en poner una y otra vez encima de la mesa cada vez más recortes y cada vez más medidas que suponen

y ataques a una vida en dignidad en esta sociedad por lo tanto por dignidad porque sabemos que movilizándose se consiguen poco a poco las cosas

no es casualidad que en un país en el que se dice y muchas veces se utiliza que la conflictividad es grande

un país pequeño pero donde las condiciones laborales hasta el día de hoy por lo menos han sido más favorables que en otros lugares algo de todo eso no únicamente evidentemente pero algo de todo eso tendrá que ver también la capacidad de movilizar de protestar

no vamos a entrar no somos nosotros quién aquí se han dicho muchas cosas sobre los sindicatos algunas de ellas nos parecen absolutamente graves merecen

los sindicatos y también los movimientos que convocan esta huelga general entendemos que se dan argumentos

para ir en contra de las posiciones de la convocatoria de esta huelga general y nos parecen que

por sí solos entendemos perfectamente nosotros y nosotras las personas de eh bildu no pretendíamos ni pretendemos que el partido popular ni siquiera el partido nacionalista vasco y como aquí se ha visto al partido socialista salgan a la calle

la huelga a pesar de que otros digan otras cosas también se convoca en contra de las políticas que están

el partido popular ustedes y también el gobierno vasco el partido nacionalista vasco aquí en contra de las políticas y entendemos que no salgan a la huelga porque en este mundo

existen clases sociales a la representante del pp le quiero decir especialmente y me ha llamada la atención que hablando de este mundo globalizado en este mundo en el que estamos viviendo de alguna manera

a nivel mundial el camino se hará también a ese respecto no es el momento

sí es el momento para recortar sí es el momento para

servicios públicos o recortar en los servicios públicos bukatzeko ustedes apuestan de alguna manera por sostener un modelo económico y social que nos lleva al abismo y hoy podemos ver cómo niegan su apoyo a la clase trabajadora y a la sociedad

a esta iniciativa tal vez sean mayoría en esta cámara lo que no significa que sean mayoría en la sociedad lo único que evidencia este debate es la lejanía y la distancia de este parlamento con los problemas las necesidades

por todo ello y como nuestro objetivo era traer este debate y ya nos hemos definido cada grupo parlamentario sobre cómo vemos esta situación retiramos la iniciativa porque consideramos que ni merece la pena llegar a la votación no porque pase nada sino porque consideramos que nuestro objetivo está cumplido

que ha expuesto la señora llanos que haya referencias sindicales en los partidos no debiera de parecerle a usted una aberración ni nada

y por lo tanto tiene esa afinidad de la misma manera que hay partidos que tienen mayor sintonía por ejemplo con organizaciones empresariales

como vemos en estos tiempos yo señora arrondo quiero pensar que usted ha entendido perfectamente la diferencia que hay entre las razones que exponen los grupos aunque todas ellas converjan en el no porque aquí no hay muchas opciones o es

a veces en el sentido del voto pero los planteamientos yo creo que son distintos y

saben entender perfectamente las diferencias decíamos que nosotros no postulamos este tipo de planteamientos en sede institucional y en el parlamento porque entendemos que son de todos no porque se dediquen a hacer política la política

contrae solo al parlamento la política entendemos que es por una cuestión

de representación institucional de todos los segmentos de la ciudadanía

un planteamiento que es de carácter conflictivo que es de presión y que lo ejerce uno de los sectores de la sociedad en este caso no un sector entero sino una parte de ese sector con una determinada

entendemos que no es de recibo y poníamos el acento en el hecho de que no era solo esa la cuestión para encontrarnos

la vinculábamos con una estrategia sindical muy concreta y le voy a poner de ejemplo algo que me ha venido a la cabeza cuando usted ha dicho eso de que las huelgas sirven para muchas cosas sí verá hubo una huelga que hizo

para acogotar a la primera experiencia socialista democrática de américa latina por lo tanto las huelgas

para algunas nobles y pías y otras aberrantes y repugnantes entonces conviene saber conviene saber y distinguir a veces en el marasmo y en la confusión general cuando parece que todo

que no solamente la formulación de ideas bien planteadas bien

escritas sobre buenos renglones no luego la praxis es otra cosa a dónde nos lleva y les he puesto de relieve el hecho

en términos generales plantee a través de su secretaria general la importancia que tiene

interprofesionales he recordado el hecho de que hemos llegado también a esta situación porque ha habido un abandono importante y hablamos de sindicatos más representativos para que esto no ocurriera y ahora que estamos ante una fecha límite como es la del fin de la ultractividad y la posibilidad de que

ahora nos acordamos de santa bárbara pero es que resulta que dentro de esa estrategia que nosotros hemos puesto de relieve o que por lo menos denunciamos como una estrategia sindical mal sana y que desde luego va contra los intereses de los trabajadores y que realmente

los del país entendemos que esa estrategia realmente amparada en convocatorias

aceptables admisibles o entendibles tienen y encierran

más peligroso porque hay una intención clara

y por eso hago la apelación a que ese sindicato de referencia debiera de pensar seriamente esas compañías esos compañeros de viaje y esas estrategias a dónde nos llevan

de que hay sectores importantes sindicales a los que les ánima seguramente una intención noble pero no a todos

sí gracias presidenta no sé si la iniciativa queda retirada o no me da la sensación de que no es posible retirar una iniciativa cuando el debate ha comenzado en todo caso

un servidor que sí por lo tanto queda retirada por lo tanto no podremos votar en contra yo más que nada bajaba a la tribuna para pedir al grupo socialista la votación por puntos de su enmienda de totalidad porque en nuestro caso sí que pensábamos votar

me imagino que decaé también esta enmienda de totalidad al quedarse retirada la iniciativa original pero bueno

son propuestas que nosotros siempre hemos defendido siempre que algún grupo

criticar los recortes injustos que aplica un gobierno u otro nosotros nos hemos manifestado a favor de criticar ese tipo de recortes y ajustes

reformas laborales no solamente la última que se han impulsado por los diferentes gobiernos en los últimos años sí que quería decir en relación al primer punto cuando se propone que este parlamento inste a las organizaciones sindicales a que busquen por todos los medios la unidad de acción sindical

no vamos a decirles a los sindicatos qué es lo que tienen que hacer cómo es lo que tienen que hacer qué pactos se tienen que alcanzar qué propuestas tienen que defender o si tienen que defender la unidad de acción sindical con el resto de sindicatos o no nosotros no íbamos a entrar en eso creo que no somos quien

ellos verán qué es lo que tienen que hacer nosotros sí que pensamos que los sindicatos en general tendrían que hacer una reflexión sobre el papel actual y

necesario hacerlo creo que los sindicatos deberían reflexionar sobre el papel que están desarrollando en los últimos tiempos pero en todo caso ya digo ellos verán y la ciudadanía en su conjunto juzgará creo que es necesario

se modernicen y obviamente que cada uno de ellos decida qué es lo que tiene que hacer o si tiene que incluso llamar a una huelga general que en nuestro caso desde luego no compartimos no compartimos en absoluto que un parlamento que este parlamento esté para llamar

en absoluto yo creo que este parlamento lo que tiene que hacer es trabajar más y mejor para cambiar la realidad para que no haya paro para que crezca la actividad económica para

para impulsar cambios para cambiar las políticas que se vienen aplicando cada uno de los grupos parlamentarios según sus puntos de vista según sus opciones creo que esa es la labor de un parlamento trabajar más y mejor

de crisis en la que nos encontramos pero en absoluto creo que un parlamento tenga que llamar ni adherirse a una huelga general gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias de nuevo señora presidenta bien voy a ser breve no porque la propuesta se haya retirado

se ha producido esa foto fija que yo le comentaba y hemos reiterado los mismos argumentos por

repetición de argumentos repetición de posiciones esa posición de eh bildu que cree que tiene el monopolio como le he dicho alguna vez

justo del modelo político económico y social conveniente lo que no sé señores de eh bildu si ustedes que se creen en esa posesión de la verdad si su modelo es el correcto por qué no tienen los setenta y cinco

y además repetición de posturas esa postura que ustedes tienen de ya lo de hablar de clases sociales

es décimonónico y usted hablaba de para qué sirven las huelgas en su primera intervención hablaba que hay que acabar con la discriminación laboral de las mujeres

nosotros podemos estar de acuerdo con ello pero para acabar con esto se lo decía las huelgas a juicio de este grupo

porque usted hablaba del día siguiente de la huelga qué es lo que hay al día siguiente de una huelga muchas pérdidas económicas muchas pérdidas económicas y creo que la situación económica de euskadi no está para tener pérdidas económicas señor itxaso usted hablaba de la referencia

y hablaba de la relación del partido popular con las organizaciones empresariales mire el presidente que llamó a los empresarios más importantes a reunirse en la moncloa

ahí pero simplemente le voy a reiterar lo que he dicho en mi primera intervención creo que la labor de los sindicatos no es hacer política

defender a los trabajadores y los derechos de los trabajadores no es hacer política no es tener esas sinergias políticas con determinados partidos y yo creo que en eso los sindicatos y lo vuelvo a reiterar aunque nuestros argumentos sean pobres porque eso también baratos se ha dicho

lo voy a dejar ahí yo no voy a calificar los argumentos de los demás pero

los argumentos nosotros creemos que los sindicatos no tienen que hacer política porque si quieren hacer política

y que sean los ciudadanos los que deciden si esa política que se propone es correcta o no es correcta lo que tienen que hacer

a esos trabajadores y usted se ha retirado la propuesta

se ha retirado porque se ha considerado que la mayoría de esta cámara no la iba a apoyar pues mire yo lo que pido desde aquí es que la ciudadanía tampoco secunda el treinta de mayo ese llamamiento

de la misma forma que ustedes como han considerado que van a perder la iniciativa la han retirado que la mayoría de esta cámara no iba a apoyar esta iniciativa que lo mismo se haga

se le respete se le respete y desde luego que los piquetes informativos sean eso informativos que si alguien quiere trabajar se le deje trabajar porque como se ha dicho aquí antes lo he dicho yo y lo han dicho otros grupos y yo lo quiero reiterar que lo que debemos hacer entre todos y lo que debemos de pedir desde este parlamento es que el gobierno vasco el gobierno de españa las organizaciones sindicales y todos toda la sociedad
trabaje conjuntamente para salir de la crisis nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

con peores datos respecto al tema del paro por lo tanto yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar aplicar esas ideas tan maravillosas que dicen tener de otra forma de hacer política acabar con esta situación de paro ese otro modelo

pónganla en marcha allí donde gobiernan y déjense de hacer demagogia

hablando de alternativas y otro modelo de hacer política si tanto existen esas ideas tan maravillosas y esa otra forma de hacer que es capaz de sacar a este país de la situación de la que esta háganlo pónganlo en práctica ahí donde gobiernan

aprovechando el viaje pues bueno se ha dedicado a todo menos a defenderla como ya lo ha dicho la señora llanos también en su primera intervención

y también del punto anterior pero ya le he dicho

mi primera intervención que la sociedad no entendería que este parlamento apoyará la huelga del día

ni tan siquiera votamos y retiramos la iniciativa

respecto al señor maneiro ha dicho que

determinar cuáles son las estrategias que los sindicatos han de seguir estamos de acuerdo con esa premisa lo único que euzko abertzaleak sí que les pedimos a los sindicatos

de verdad a ejercer sus funciones y a defender los derechos de los y las trabajadoras y que dejen la política para los representantes políticos

que en vez de parar para euzko abertzaleak y la señora llanos también lo ha mencionado lo que tenemos que hacer es trabajar acordar medidas que pongan freno a la destrucción de empleo

a fin de que se vuelva a generar empleo eta bukatzeko bakardadeaz aritu zarete gaur

itotzen dituzten finantza arazoak konpontzen por eso la iniciativa del grupo socialista y las enmiendas del resto de los grupos al menos de los que hemos transaccionado cosa que agradezco parten de una misma necesidad ayudar a las industrias culturales a resolver los problemas financieros

problemas que están relacionados con la crisis económica que también sufren el resto de las empresas pero que en el caso de la cultura tiene algunas particularidades una está relacionada con el imaginario social muchas veces cuando se habla del mundo de la cultura se piensa más

y sin embargo lo es porque tanto muchos aspectos de la creación como la producción y la distribución de los productos culturales

con las mismas necesidades y problemas que cualquier otra por eso es importante que abordemos la situación desde esta perspectiva para que las soluciones sean las adecuadas el sector cultural vasco además no es de poca importancia desde el punto de vista económico las empresas culturales son

y el dos coma siete por ciento del empleo total pero tienen un problema entre otros el noventa y cinco por ciento de esas empresas tiene menos de nueve empleados

uno o dos empleados lo que indica que es un sector constituido

una red todavía débil que es preciso proteger crear esa red

y difusión de nuestra cultura es un trabajo difícil de años que se puede romper para mucho tiempo si no se atiende adecuadamente desde las instituciones y ese es el peligro porque durante los últimos años la pérdida de empresas en el sector

en el comercio de los productos culturales y en las actividades de diseño creación artísticas y de espectáculos de ahí la importancia de medidas de choque como la del bono cultura puesta en marcha la pasada legislatura

creo muy importante mantener las actuaciones que ya están en marcha

la atención a la creación básica en las fábricas de creación donde se promueve y modelos de trabajo también los planes de modernización e innovación tecnológica de cultura dos punto cero

o el mantenimiento a través de subvenciones de las entidades compactantes como son

o el apoyo a la creación de redes como zineuskadi también el apoyo a los canales de distribución con programas paliativos puestos en marcha la pasada legislatura como bono cultura y kultura bultzatuz quiero enfatizar esto de los canales de distribución porque probablemente es donde están ahora mismo los mayores problemas

si la distribución se nos muere la situación es tan mala que además de mantener

es imprescindible introducir otras nuevas fuera de las líneas subvencionadas o subvencionales habituales que impidan el enorme deterioro que está sufriendo la trama de la producción cultural el objetivo debiera ser

y ofrecer a las empresas culturales pymes en su mayoría programas concretos que les ayuden a solucionar los problemas financieros de los cuales el del crédito es como el resto de los sectores

en cualquier caso hay que dejar bien claro que no se está proponiendo reducir

sino una ampliación de las ayudas mediante la apertura de líneas de crédito que completan las necesidades de financiación del sector en definitiva

la transacción que hemos alcanzado el grupo socialista nacionalistas vascos y populares vascos incide en los principales problemas que he apuntado por una parte la falta de liquidez de muchas empresas que proponemos paliar

cultural aquí me parece fundamental lo que entiendo como un cambio de actitud del pnv

esta iniciativa está corrigiendo la decisión de su gobierno de eliminar este año los prestamos a la producción audiovisual estaba en el presupuesto del dos mil doce con siete millónes de euros y había desaparecido del proyecto de presupuestos para este año dos mil trece entiendo que ahora el gobierno aplicará

del acuerdo de hoy es que cualquier plan debe contemplar la distribución exhibición para lo cual es imprescindible un acuerdo

y los ayuntamientos y lo que es más importante el efecto de esta iniciativa es que si sostenemos las empresas estaremos ayudando al mantenimiento del empleo cultural

pero que en el sector cultural tiene además el agravante de que hay muchos profesionales

en cuanto a las coberturas sociales y sin expectativas próximas de mejora del sector en cuanto a la valoración del euskera

se incrementa el diez por ciento de los puntos a los proyectos en euskera

se incluye también por ejemplo en las ayudas a la promoción cultural con un treinta por ciento en la ponderación al fin lo que se pretende es que el gobierno utilice las ayudas financieras para combinar la ayuda a la distribución

a la cultura y el mantenimiento del empleo cultural hau da nahi duguna da gobernuak erabil ditzala laguntza finantzieroak

enpleguaren mantenimenduarekin konbinatu ahal izateko por eso les pido el apoyo a esta transacción también

entendemos que el impulso es fundamental en impulso de todos eskerrik asko

parlamentarios bien mi grupo considera

o industrias culturales y creativas como mejor se conocen en la actualidad y por eso ha sido fácil llegar a una enmienda de transacción el término

la creación la producción la comercialización de contenidos creativos que contienen

incluyen tradicionalmente los sectores editorial audiovisual televisión cine multimedia artes escénicas patrimonio artes visuales artesanía el término

en las que el producto servicio contiene un elemento artístico o creativo sustancial

incluyen a las industrias culturales tradicionales y las actividades

el análisis y estudio de esta proposición no de ley nos ha permitido conocer más afondo algunos aspectos de política cultural

son un elemento interesante también de futuro hay profundas reflexiones de última elaboración

esencial en la sociedad actual además en política cultural sigue siendo y en esto se ve

consensos sobre la definición de los objetivos a conseguir y los medios a emplear para conseguirlos por ello hay que promover una mayor coordinación

y la colaboración entre administraciones públicas y agentes culturales esa es una de las claves un interesante trabajo de la fundación ideas sobre

de primer orden en la competitividad de la economía española

potencial como detonantes de procesos de innovación

y talento creativo que son definitorios de ese sector de actividad además al tratarse de un sector

incremento de empleo lo cual es importante de calidad un impulso notable de la economía basada en la

ciertamente relevante y digno de que pueda ser apoyado

culturales son fuente de innovación crean puestos de trabajo y actúan de interface entre las distintas actividades sectoriales además son una fuente de ventaja competitiva

en el desarrollo de la innovación no tecnológica y poderosos motivadores de la innovación tecnológica también factores de desarrollo territorial y local y fuerza

yo creo que albergan factores económicos ciertamente

la importancia y el potencial de las industrias culturales y creativas radica

en varios factores la riqueza cultural de euskadi

la riqueza idiomática la demanda de productos y servicios relacionados con la cultura cada vez más la oportunidad que representan los procesos de digitalización

de la creación y del proceso de convergencia en la producción distribución consumo cultural donde las empresas vascas y españolas deberán tener capacidad de captar clientes a escala internacional

en ese sentido sobre ese plano la enmienda

trata de promover no estamos hablando simplemente de una política subvencional no hay algo más es decir yo creo que está bien claro como hemos dicho en el punto número uno que aplicar un programa de ayudas financieras

inversión vinculada al crecimiento empresarial bueno ahí están las claves vinculada al crecimiento empresarial

como a las de nueva creación para apoyar inversiones destinadas a ampliar líneas de negocio la innovación tecnológica bienes de equipo activos inmateriales

de ligar la actitud económica de favorecer a los emprendedores y de que los poderes públicos en esa colaboración que nosotros hemos puesto entre los poderes públicos y los agentes culturales pues pueda tener ese vehículo efectivamente en ese sentido en la

con las entidades financieras forma parte de lo normal en relación con el crédito porque estamos hablando de empresas y de emprendedores

administraciones públicas y los agentes culturales es una de las claves que nosotros poníamos de manifiesto al principio de esta intervención y efectivamente son elementos que yo creo que son importantes las industrias

por su escasez de financiación son actividades a veces

de activos intangibles es una característica que impide muchas veces ese paso a la financiación vamos a entender que esto es un paso adelante en una época de crisis en una época de ajustes de recortes

presentado y retirado sufría mucho en relación con la financiación pública

relevantes que son importantes que son creadoras de riqueza creadoras de empleo

en esta enmienda un actitud decidida por parte del ejecutivo al que se le insta

la propuesta inicial presentada por el grupo socialista se introdujo de manera integra en el pleno monográfico de empleo celebrado en esta cámara el pasado

y fue rechazada con los votos de euzko abertzaleak y la abstención de bildu grupo popular y upyd no obstante y teniendo en cuenta que el programa de reactivación del empleo

aunque no dirigidos exclusivamente al sector cultural y además

hemos llegado a un acuerdo lo cual demuestra que compartiendo el fondo del asunto si hay voluntad

a otros temas que se tratan en este parlamento ya en el programa electoral del partido nacionalista vasco

como elementos de referencia generadores de contenido y tractores de creación de empleo e innovación y este compromiso electoral ha tenido su traslación al programa de gobierno dos mil doce dos mil dieciséis de esta décimo legislatura

abierta y plural tratando como primer objetivo de trabajar en una política cultural de encuentro coordinación y colaboración interinstitucional

bajo un marco compartido fórmulas de desarrollo de la política cultural el segundo objetivo es la reordenación de los recursos públicos para una mayor eficiencia y una mejor respuesta a las necesidades de los agentes culturales y la ciudadanía y el tercer objetivo expresamente

con varias iniciativas concretas algunas de las cuales son impulsar la innovación la internacionalización y la modernización continua en el sector como instrumento de dinamización económica y de generación de empleo y redefinir

las líneas de ayuda y financiación a la cultura adaptándolos a los nuevos marcos de creación producción exhibición y negocio beraz uste dut gai honetan

legezbesteko proposamen hau aurkeztu izan ez balitz ere y no solo queda meridianamente reflejada esa voluntad sino que ya se están dando pasos decididos en este sentido como la reciente participación de representantes del gobierno vasco el pasado mes de marzo defendiendo en bruselas la importancia

la apuesta por la cultura y la creatividad como uno de los sectores con más potencial para dinamizar el crecimiento e incidiendo

las autoridades locales y regionales en esta materia se está trabajando en un programa de apoyo cultural europeo europa creativa dos mil catorce dos mil veinte

de centrar los esfuerzos en impulsar y reforzar el potencial

y se pretende reforzar también el acceso a la financiación a través de iniciativas alternativas que impulsen la innovación y la competitividad del sector cultural y creativo por lo tanto

y es un objetivo compartido desde tres puntos de vista en primer lugar como impulso y potenciación de nuestra cultura la cultura vasca

a la comunidad autónoma con perspectiva de igualdad de género y apoyo decidido al uso y promoción del euskera como se recoge en el último párrafo de la enmienda transaccional

y finalmente como generador de empleo estamos hablando de un sector que representa el cuatro coma cinco por ciento del producto interior bruto de la unión europea y mantiene entorno a ocho millónes y medio de trabajos en la unión europea y que en euskadi según los últimos datos de junio del dos mil doce aunque referidos al ejercicio dos mil nueve se cuantifican en que la industria cultural vasca en la comunidad autónoma del país vasco genera casi tres mil doscientos puestos de trabajo y moviliza cuatrocientos sesenta y tres millónes de euros

a la actividad económica dicho esto no es menos cierto

y que somos conocedores de las dificultades añadidas por los créditos otorgados en los últimos años

y la situación de nuestras empresas culturales debe llevarnos a reflexionar y replantear las herramientas hasta ahora utilizadas por citar algún ejemplo concreto que acredita lo mencionado si en dos mil cuatro se concedieron créditos a las empresas

en dos mil doce bajaron a poco más de medio millón y no es debido ni es proporcional a una rebaja presupuestaria

están pendientes de convocatorias anteriores que los adjudicatarios no pueden devolver quedando endeudados con hacienda al endurecerse las condiciones

muchos menos proyectos que podían optar a la financiación creemos que se trata por lo tanto de un tema muy complejo ya que si no se es muy riguroso

y si se es muy riguroso con la imposibilidad de acceder a las ayudas y que hay que hacerlo bien porque aun valorando positivamente los esfuerzos realizados en el pasado

de productoras importantes que se encuentran en difícil situación por las deudas contraídas que no pueden devolver entendemos también que para buscar una solución

de la enmienda transaccional y aquí juega un papel importante el consejo vasco de la cultura a nivel interinstitucional donde están representado las diputaciones forales las capitales y eudel

correspondientes sectoriales se debe ir trabajando junto con el sector entorno a definir un modelo de financiación que realmente sea útil por otro lado y como comentaba antes y mientras se procede a este necesario periodo de reflexión con el sector la línea de financiación que abierto el gobierno a través del departamento de hacienda

por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas personas y empresarias individuales

ya no establece mínimos en cuanto a número de trabajadores etcétera por lo que pueden optar desde ya

por lo tanto para finalizar la financiación en las industrias culturales tanto para su crecimiento adaptación tecnológica

es un tema importante que hay que abordar eta esan bezala

la disminución en la concesión de créditos es el síntoma precisamente no de que hubiera menos presupuestos porque no se cubría es decir no había demanda sino de la dificultad de las empresas

quien como en otros sectores industriales como el resto de los sectores actúen mediante avales que permitan a las empresas que tengan proyectos viables después de analizarlos el acceder a créditos

señora ubera con todo el respeto pero yo le he visto

el tono o el hábito de sus intervenciones intervenciones más sólidas menos evanescentes que las de hoy por lo tanto lo achaco a cómo han enfocado ustedes

el tema este el asunto de la cultura porque estamos estamos hablando también en su iniciativa

que es una enmienda a una iniciativa de financiación de industrias culturales y luego hablan de introducir en el presupuesto

es la mayor lo que se propone luego no estamos hablando del concepto de cultura

del empleo cultural si a usted eso no es su prioridad

su prioridad que lo sepa el sector porque es que si venimos a hablar de empleo cultural y están hablando de concepto de cultura

eso lo tenemos muy hablado y fíjense hasta tal punto que no ha sido capaz de más allá de generalidades y lugares comunes de introducir algo que concrete su diferencia

alcanzado el resto de los grupos y es que a mí y de verdad que lo lamento pero me da la impresión de que aún practican ustedes un cierto

cualquier propuesta si sale de ustedes es

pues mire todo lo que ha dicho o está en marcha o no corresponde a lo de hoy habla usted de pluralidad pues bienvenida al club porque toda la pasada legislatura

cuando había otros grupos que no estaban por esa defensa del respeto a la pluralidad y se practicó hasta tal punto que

introdujo ese concepto como cambio sustancial en la política cultural del anterior gobierno porque hablaba de las culturas individuales personales de la conciliación y convivencia

individuales de cada persona habla usted de espacios públicos de investigación hombre las fábricas de creación son conocidas han tenido éxito de hecho es un programa que se mantiene por la enorme demanda que tiene el gran éxito que tiene en el sector

ni menos que una fábrica de creación los espacios

como el programa kultura dos punto cero los espacios en los que se encuentran los creadores los nuevos creadores todo eso

las fábricas de creación son eso dónde está la diferencia de su propuesta dice que es digo porque

la transformación profunda que reclama yo entiendo que respecto a esta propuesta conceptualmente se dirigirá usted al gobierno dónde está porque yo no la veo sí habla usted aparte de

y que se incorpore en el presupuesto habla de priorizar las producciones o expresiones artísticas de aquí le aseguro que con muy buena voluntad he tratado de traducir qué significa de aquí porque en las convocatorias

se habla de personas que hayan nacido aquí en euskadi estén donde estén de personas que lleven trabajando un año empadronadas en euskadi para garantizar

pero se introducen criterios que hablan de características de nuestra cultura de nuestra actividad de nuestras empresas pero todo eso tiene un límite

habla de que se prioricen aquellas cuyo objetivo único

único objetivo sea el beneficio económico el beneficio económico es el motor de cualquier empresa honrada que pague impuestos

claro es un motor en nuestra sociedad cómo es que no nos preocupamos también fíjese también digo

económico o es una empresa en quiebra o es una fundación sostenida con fondos públicos pero las industrias creativas

tienen que tener un beneficio económico para poder vivir honrado legítimo tasado

de qué estamos hablando estamos hablando de defender a nuestras empresas culturales y estamos hablando de defender el empleo en euskadi cíñanse a eso por favor y harán un servicio a todos y entonces se encontraría con nosotros y ya lo

sí muchas gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño muy brevemente yo creo que

la lectura del texto de la enmienda de transacción es muy clara en relación con esa cuestión puntual y sectorial del gran concepto que es la cultura yo creo que

bildu trata de meter el concepto general de la cultura en una pura labor de confusión yo creo que es

de intervenirlo todo desde los poderes públicos que tiene esa

todo y estamos hablando fundamentalmente en esta iniciativa de iniciativa privada

y estamos hablando de elementos favorecedores para que esa iniciativa privada

que hemos visto dentro de lo cultural se regenere se mueva

la financiación en este caso como ayuda pública es uno de los factores pero podríamos hablar del mecenazgo podríamos hablar de las empresas que no necesitan financiación de los poderes públicos ni ese tipo de ayudas pero lo que estamos hablando fundamentalmente en esta iniciativa privada y algunos lo que quieren es controlar

zure baimenarekin jesarlekutik gauza bat esateko señor reyes creo que

las asignaciones de esta línea de financiación anteriores no solo se ha debido a la rebaja presupuestaria sino a las dificultades que están atravesando y a los requisitos que hay que cumplir lo cual también evidencia que las herramientas utilizadas hasta ahora no han resultado todo lo útiles que se pretendían y por eso

es necesario trabajar de manera coordinada con todas las instituciones y el sector a fin de que las líneas de financiación que se implementen

presidenta pediría a los grupos que han firmado la enmienda transaccional la votación por puntos si fuera posible por un lado los tres primeros y por otro lado